honen arduraduna ante la multa de treinta millónes de euros impuesta por el tribunal de justicia de la unión europea a la que vamos a tener que hacer frente desde las instituciones vascas es decir

entre todos y todas no valen evasivas ni justificaciones baldías y por supuesto no valen los infantilismos los castillos en el aire

comodines temáticos que en este país parece que valen para un rato y un descosido

quiere saber el porqué de esta multa qué ha pasado y quiénes son los responsables el partido nacionalista vasco principalmente debe aclarar por qué desolló el mandato de la unión europea para beneficiar a unos pocos la gente quiere escuchar a los responsables de que entre todos

de treinta millónes de euros reconociendo sus actos y decisiones y lo que no quiere es oír al lehendakari hablando de almas o al diputado foral de bizkaia haciendo cuentas tramposas

fiscales en definitiva echando balones fuera todos los días lo que no podemos permitir es que por la desidia de algunos ahora

ahora que la ciudadanía lleva ya demasiado tiempo soportando recortes ahora justo ahora tengamos que pagar treinta millónes de euros de multa

y esa esa es la razón de la multa impuesta por el tribunal de justicia de la unión europea

iniciaron en el año dos mil uno una táctica de dilación una táctica de huída hacia adelante llegando a tomar el pelo a las autoridades europeas como estas mismas han llegado a reconocer con el envío de documentación inservible

en un alarde de irresponsabilidad que no se puede justificar bajo ningún concepto porque se pongan como se pongan

y todas para beneficiar a unos pocos una vez más han puesto los intereses de unos pocos que casualidades de la vida siempre son los mismos los que más tienen por encima del interés general

pueden utilizar todo tipo de palabrería para envolverlo pero la realidad es esa isuna berez larria da oso baina larria da

impuesta por la falta absoluta de medidas para dar cumplimiento a la sentencia del dos mil seis tiene suficiente entidad tanto económica como política

el foco se ponga en la responsabilidad de quien decidió instaurar unas ayudas manifiestamente ilegales y lo que es aún más grave hizo caso a los requerimientos de europa sin tener en cuenta el interés general de la sociedad señoras y señores no es tiempo de excusas es tiempo

muchas gracias señora presidenta nosotros de la proposición que presenta bildu

hay una cosa en la que sí estamos de acuerdo que es que evidentemente hay que pagar la multa y hay que pagarla con criterios razonables y racionales

y aquí hay varios temas de los que habría que hablar primero porque la multa que son treinta millónes de euros que no es una cantidad pequeña tiene responsables de por qué se nos multa y es evidente que se nos multa porque se ha incumplido los requerimientos reiterados durante muchos años de la unión europea

dando respuestas pues de no sé qué palabra utilizar pero cuando la unión europea pide

que dé el listado de empresas beneficiarias y la respuesta de una diputación en concreto es que los busque la unión europea en el boletín oficial

que es lo que hizo por ejemplo la de bizkaia en su momento

entre instituciones o simplemente de mostrar cierto respeto pero desde luego lo que no es es hacer amigos

y aquí nos lo han explicado nos lo han explicado y es evidente que esa gestión tiene unos responsables directos de un partido político que es evidente el pnv y que es el que gobernaba en las tres instituciones cuando se produjo

porque de los grupos que estamos en esta cámara yo sí sé lo que voté cuando se planteó el tema de las vacaciones fiscales y yo no voté a favor pero no por lo que se ha dicho

que se pusiera al lado de otra que ya existía y que hiciera lo mismo no pagara impuestos y la de al lado sí

y era un planteamiento tan raro y una competencia tan rara que a nosotros no nos parecía que eso podía encajar primero en europa y segundo que fuera beneficioso para las empresas de esta comunidad autónoma pero también quiero recordar por qué la unión europea entra a valorar si son buenas malas legales o no las vacaciones fiscales porque la denuncia en bruselas la hace fagor

en álava y allí es cuando se declaran ilegales y por eso se declaran ilegales

entonces aquí hay responsables directos de eso sí y hay beneficiarios incluso de las resoluciones de la unión europea y hay paganos

aquí hay beneficiarios que han sido las administraciones vascas que a cuenta de tener que recuperar las ayudas fiscales han ingresado en plena crisis económica más de setecientos millónes de euros que se han repartido setenta por ciento gobierno vasco

y ha habido perjudicados y estamos de acuerdo con el último inciso

que hay que garantizar la seguridad jurídica de los contribuyentes y hay perjudicados hay perjudicados en más de setecientos millónes que son las empresas que han tenido que devolver el dinero esos son los primeros perjudicados y luego hay otros perjudicados que somos todos los ciudadanos que tenemos que pagar treinta millónes de euros

gestión del asunto no ya de la aprobación sino de la recuperación de las ayudas económicas y aquí ya cuando hablamos de mala gestión quiero recordar que esta legislatura la empezamos yo le hacía una interpelación al lehendakari

o habíamos perdido veintisiete millónes de euros por mala gestión de fondos europeos ahora tenemos la multa de treinta millónes de euros que esperemos que la paguemos pronto y además no devenguen intereses

y por eso hemos planteado la enmienda transaccional que hemos planteado y a esta tenemos que sumarle otros veinte millónes de multa por el asunto de magefesa con lo cual solo en temas con la unión europea en estos dos años que llevamos de gobierno pues tenemos un saldo digamos negativo de setenta y siete millónes de euros solo con estos tres asuntos

con nuestros impuestos y por lo tanto la gestión que se está haciendo que se ha estado haciendo

porque esa gestión de momento nos está costando los treinta más los veinte más los veintisiete millónes de euros y es evidente que aquí también

decíamos bien clarito que se pague cuanto antes que se pague cuanto antes porque como

se acabe el procedimiento y lleguemos dentro de ocho nueve meses a pagar nos vamos a encontrar con que no son hogeita hamarmillónes de euros sino que son treinta millónes más los intereses

pagar intereses en este tema pero también nosotros planteamos que evidentemente el criterio de reparto de la multa entre las instituciones tiene que ser correlativo al de los beneficios si a la hora de repartirse los beneficios existe

parece que a la hora de repartirse los gastos habrá que aplicar el mismo sistema porque ya solo faltaría que alguien plantee y alguna voz hemos oído por ahí de que no este no es un tema del gobierno este sí es un tema del gobierno es un tema del gobierno desde el principio

estaban otros y otros fueron los que los aprobaron no fuimos nosotros desde el minuto uno y por lo tanto aquí que cada palo aguante su vela

con lo que nos ha ocurrido y hemos llegado a un acuerdo con el grupo nacionalista vasco y hemos llegado a un acuerdo una transacción

en la enmienda es decir que se llegue a ese acuerdo de que a la hora de pagar los gastos se apliquen los mismos criterios que para llevarse los beneficios fiscales de las recaudaciones

y eso es lo justo y esperemos que eso se haga así y no solo que se haga así sino que el pago se haga cuanto antes y no tengamos que esperar a pagar todavía por otra negligente y nefasta gestión además de los treinta millónes de euros

conocemos los hechos históricos del asunto que se debate las cosas que han ocurrido en los últimos veinte años evidentemente la conclusión definitiva que es la multa impuesta una multa de treinta millónes de euros como resultado de una serie de decisiones tomadas claramente equivocadas consecuencia también de la actitud absolutamente irresponsable de determinados representantes políticos y efectivamente hay que señalar que esta multa la van a pagar la vamos a pagar los ciudadanos vascos

una multa de treinta millónes de euros que pagaremos

consecuencia de la actitud absolutamente irresponsable y tramposa de determinados representantes políticos de determinadas instituciones vascas en los últimos veinte años más allá del discurso realizado por la portavoz de eh bildu creo que la propuesta

de lo importante o al menos se adentra en terrenos que creo que no son destacables en el día de hoy en fin se señala como estrategia una decisión política diseñada para que los empresarios pagaran menos y además de ello

en fin se apuntan otras cuestiones que creo que no importan en el debate de hoy evidentemente cada grupo puede plantear lo que quiera se podría discutir de alguna de las propuestas que plantea eh bildu pero en nuestra opinión aquí lo importante no es tanto que fue o fuera una decisión política diseñada

sino sobre todo que se tomó una decisión y que se aprobaron unas que resultaron ilegales que eran ilegales y que después las diputaciones forales en lugar de tratar de recuperar esas ayudas lo más rápidamente posible lo que hicieron fue básicamente tratar

al conjunto de la ciudadanía en fin quizás pensarán estos representantes políticos que europa

imperan no solamente la corrupción y la corrupción política sino donde impera esa forma de hacer las cosas y esa manera de en fin no cumplir la legalidad vigente pensando que todo puede pasar de largo y que las autoridades

lo relevante sabemos también quiénes son los perjudicados ya se ha apuntado evidentemente los ciudadanos que vamos a ser quienes vamos a pagar

en estos veinte años las empresas que se beneficiaron de ayudas supuestamente legales y que tuvieron que devolver las ayudas años después también han sido claramente

de euskadi como consecuencia de este comportamiento absolutamente irresponsable y tramposo de determinadas instituciones por lo tanto

es que se aprobaron unas ayudas ilegales la negativa posterior de las diputaciones forales a recuperar las ayudas dando largas y engañando o tratando de engañar a la unión europea incluso se llegó a decir que esas ayudas

pretendiendo engañar a la unión europea y retrasando por lo tanto la recuperación de esas ayudas como consecuencia de eso lo que tenemos es una multa millónes de euros y además en los últimos días hemos asistido a una carrera de determinadas declaraciones absolutamente impresentables muy poco edificantes

bilbao que venía a pedir a la unión europea que en fin que vigile menos o cuando el señor venía a plantear que esta multa impuesta por la unión europea viene de una unión europea sin alma pretendiendo desviar la atención de lo importante

mal y que por lo tanto hay que asumir esa responsabilidad y que hay que comprometerse a que en el futuro esto a ocurrir por lo tanto hemos sido víctimas de políticos irresponsables y tramposos que pensaron que se podía engañar a la unión europea

un debate en relación a quién tiene que devolver o quién tiene que pagar la multa de los treinta millónes de euros

de distintos grupos nosotros no queremos entrar en guerras territoriales para nosotros lo importante es lo que acabamos de decir

finalmente los ciudadanos van a ser quienes pagarán esa multa de treinta millónes de euros no queremos entrar en guerras territoriales pero

si observamos qué es exactamente lo que ha ocurrido y si observamos cuál es la razón por la cual se impone multa de treinta millónes de euros la conclusión en nuestra opinión es que esta multa deberían pagarla las diputaciones

de ellas a la hora de recuperar esas ayudas porque por eso se pone la multa de treinta millónes de euros por lo tanto viendo el asunto

la conclusión es que esta multa de treinta millónes de euros deberían pagarla las diputaciones forales en función de la tardanza en la que cada una de ellas incurrió a la hora de recuperar estas ayudas no me parece mal el planteamiento realizado por damborenea en relación

y racionales pero yo creo que si dejamos a un lado intereses partidarios

institucionales creo que todos podríamos estar de acuerdo en las razones por las cuales se impone esta multa y se impone la multa porque las diputaciones

no quisieron recuperar las ayudas a tiempo

nuestra enmienda de totalidad por un lado

a pagar sin excusas de ningún tipo evidentemente

esta multa sin excusas y cuanto antes y también queremos que este parlamento censure la puesta en marcha de las denominadas vacaciones fiscales

así como seguramente sobre todo la tardanza injustificable e irresponsable en la recuperación de las ayudas empresariales por parte de las diputaciones

esta es nuestra enmienda hemos leído la enmienda transaccional a la que han llegado el partido popular y el partido nacionalista vasco

que la repercusión de la imposición al estado por parte de europa de esta multa

un impacto financiero de carácter excepcional y extraordinario esto es cierto pero también parece evidentemente que esta enmienda de transacción

no quiere censurar la actitud de distintos representantes políticos

no señala a los responsables no pregunta por los responsables y parece olvidar también que finalmente los paganos vamos a ser los ciudadanos además en ese segundo punto se señala que esta multa se pague conforme a lo que se acuerde

de finanzas en fin nuestra posición ya digo es pretender no incendiar no incentivar las luchas territoriales
y por eso nos ceñimos a lo que dice exactamente nuestra enmienda de totalidad gracias eskerrik asko maneiro jauna

saber quiénes son los responsables malos gestores

eusko alderdi jeltzalea eta alderdi sozialista por cierto maneiro solo una cosita

que su líder la líder de upyd rosa diez tenía un cargo muy importante en este gobierno del lehendakari ardanza consejera ni más ni menos para que venga usted a decir aquí

fueron desacertadas su líder su líder miembro del gobierno bien

que la mejor política industrial es la que no existe beraz estatutik gainera

oso deigarria da resulta paradójico el doble lenguaje de quien hoy

aquí hemos oído más de una vez cómo se está pidiendo al gobierno vasco y a las diputaciones y a las instituciones vascas que apoyen que subvencionen

que nos pidan que estemos haciendo lo que entonces se decidió hacer sabiendo ahora que eso no se puede hacer que nos pidan que volvamos a hacer lo mismo y nos critiquen como están criticando las decisiones que en un contesto francamente difícil en euskadi se adoptaron

hay que tener poca vergüenza hay que tener poca vergüenza baina gainera

señora presidenta señoras y señores parlamentarios señora gorospe de tono ha estado fantástica

pero razones ninguna autocrítica menos y capacidad de respuesta al problema nada de nada

tratando este asunto sobre todo porque las vacaciones fiscales la multa sobre las vacaciones fiscales y todo lo que rodea a las vacaciones fiscales se ha terminado convirtiendo en un escándalo político y como es un escándalo político y un escándalo económico

y este parlamento tiene que dar cuentas y tiene que rendir cuentas a la ciudadanía de las cosas que se han hecho

lo que se ha hecho con las vacaciones fiscales es un mal uso del concierto económico y esto hay que asumirlo porque algunos además lo quieren volver hacia otro sentido no se ha hecho un mal uso

lo que se ha hecho es desafiar leyes y normas que nos afectan sabiendo que se desafiaban pero se han desafiado lo que se ha hecho es

política económica fiscal normativa un espectáculo un espectáculo para contentar no se sabe qué ego político o qué dogma político

lo que se ha hecho es querer convertir ideas y decisiones nacionalistas

son superiores y son prevalentes aquí fuera de aquí en todos los lugares y que no están sometidas a ningún control y a ninguna legislación se han saltado todos los preceptos legislativos de todos los sitios y todo esto por defender un dogma nacionalista todo lo que se ha hecho

a la unión europea esto es lo que ha ocurrido y esto está hasta reflejado en las sentencias y en las vistas orales de los juicios

quien ha liderado esta estrategia porque además todo esto se hace a costa de los recursos públicos a costa de los impuestos de los ciudadanos

arcas económicas para hacer políticas públicas que además ahora tienen que pagar multas las multas a las que ustedes nos han llevado y todavía como

y nadie ha pedido disculpas por esos errores y usted se permite responsabilizar a todo el mundo pero no hace una autocrítica de esas responsabilidades

se equivocaron que además son más responsables que nadie por no decir casi responsables exclusivos de todo esto que ha ocurrido

han querido difuminar en múltiples cruces de responsabilidades de abroncamientos a terceros y de debates envolventes sobre quién quiere pagar la autoría de este

y desgraciadamente el problema no es quién paga porque quién paga está claro la ciudadanía el problema efectivamente es que pagan los ciudadanos quizás lo único que se puede discutir ahora es de qué caja sale pero que más da de qué caja salga es que es lo más relevante de qué caja sale

de tres o de cinco si de todas las cajas todas las cajas se nutren de los recursos de los ciudadanos ojalá pudiéramos aquí en este parlamento discutir quién tiene que pagarlo porque si pudiéramos discutir quién tiene que pagarlo yo propondría que lo pagaría el partido nacionalista vasco

a esta situación que es quien no quiso escuchar a nadie cuando se nos metió en este lío a nadie absolutamente a nadie

aceptar algún planteamiento alguna idea alguna consideración alguna prevención y se dieron y muchas se dieron pero no era mucho más importante desarrollar esa idea

y de que el concierto económico y los vascos lo podíamos todo y lo podíamos todo

y por eso quien no quiso escuchar a nadie quien dio una patada a las sentencias quién se mofó de las sentencias es quien debiera de pagar todo esto pero no va a ser así y además y desgraciadamente el problema no son treinta millónes de euros

más gastos multimillónarios de defensas de lujo que no se sabe para qué han servido y aquí estamos aquí estamos después de haberle enviado

josé luis bilbao diciéndole a la unión europea oiga quieren saber ustedes quienes fueron los

beneficiados de las vacaciones fiscales a qué empresas les afectó pues métanse en la furgoneta y busquen

con bastantes cajas de papeles para que ustedes puedan buscarlos y claro cuando uno va por la vida así cuando uno tiene ese sentido de la responsabilidad institucional cuando esa visión de cómo se tiene que relacionar con otras instituciones de cómo tiene que tratar a los tribunales de cómo tiene que responder a los requerimientos judiciales

y eso sí las multas a pagarlas a escote efectivamente aquí se creó una figura fiscal para una competencia

entre territorios y empresas y además de crearse esa figura fiscal desleal además se trató de ocultar y cuando todo esto salió

se empezó a llevar las manos a la cabeza pero ese alguien ya era incapaz de velar

jurídica y por garantizar la seguridad jurídica de los contribuyentes los responsables de estas barbaridades son los que planificaron esa estrategia de pase foral

y fueron ustedes fue el partido nacionalista vasco fueron los responsables máximos de las instituciones del partido nacionalista vasco de unas ayudas fiscales

y por supuesto que hay como ya se está señalando aquí nombres y apellidos responsables que están y que siguen además todavía en las instituciones y que además no solamente como ya he dicho diseñaron una mala herramienta fiscal sino que incluso quisieron

ridiculizar al propio tribunal como así ha señalado

que se vio recientemente es mentira que la unión europea haya cuestionado la capacidad de los territorios históricos para conceder ayudas fiscales a las empresas

lo que la comisión europea impugnó y el tribunal de justicia confirmó es que esas ayudas fiscales concretas se concedieron vulnerando normas europeas de competencia

lideró la negativa de recuperar las ayudas sabiendo que tenía que hacerlo por sentencia firme y ahora estamos con esos treinta millónes y con todo lo que hemos gastado

las cortinas de humo las frases huecas la europa sin alma

de esta multa a nuestras arcas cuando esto se pudo y no se quiso evitar y por lo tanto ahora lo que corresponde seguir dilatando las cosas no es seguir detrás de la enmienda transaccional que han pactado no es seguir dejando en el aire cuál va a ser la solución lo que

y den la solución digan cómo hay que hacerse y nosotros podamos valorar si esa es una solución buena o mala pero todavía hoy desgraciadamente no solamente

no solamente no se sienten responsables de este desaguisado que solo ustedes lo han provocado sino que todavía hoy no tienen una solución a este problema y esto es grave y muy grave

de responder a este problema con una solución de verdad y no con cortinas de humo eskerrik asko prieto jauna

viene usted más revolucionada que nunca no para defender su postura sino para repartir

típica defensa de la derecha más rancia que la responsabilidad es de todos

la responsabilidad es de todos y nosotros no hemos hecho nada bueno

en esas cuestiones yo tengo muy claro cuál es la postura y cuál es mi postura clarísima pero

y lo sabe perfectamente porque la orquestaron ustedes en sus despachos y usted me habla de los empresarios pero si usted aquí me ha hecho el discurso de confebask

mismos argumentos mismas palabras mismo fin exactamente el mismo

deben de tener el mismo escribano porque es exactamente lo que usted ha hecho hoy aquí si usted quiere seguir en esa posición

que no hay ningún problema porque los demás pues ya seguiremos donde tenemos que seguir porque sus argumentos son los de siempre

en mi intervención nada más empezar que no es momento de evasivas no es momento de infantilismos de contarnos historias

ahí ahí se ha ido usted a evasivas a contarnos castillos en el aire

que cuando estamos hablando de una cosa tan seria su partido diga que es que europa no tiene alma o sea de verdad eso es serio

mejor ni hablamos porque hasta tuvo que tener un rifirrafe con los empresarios

para que en público tengan que tener semejante rifirrafe sinceramente esto es grave muy grave

no hacer caso no hacer caso y dilatarlo y dilatarlo y seguir hasta el infinito

porque yo lo valgo esa es la postura de ustedes del partido nacionalista vasco

treinta millónes de euros de la comunidad autónoma en este caso treinta millónes de euros y para ustedes lo único que importa es venir aquí y repartir

vamos a asumir la responsabilidad para qué vamos a hacer autocrítica no no pnv treinta años haciéndolo bien pues claro que habrá habido cosas correctas y cosas incorrectas pero por favor no tengan

que era necesario hacer esto por favor argumentos un poco más sólidos

no lo sustenta para nada no se sustenta ese argumento porque se ha visto a posteriori a quién benefició esto

dónde está el resultado positivo ninguno lo sabe que no es verdad

lo único que ha supuesto es que hoy aquí nos encontramos que tenemos que pagar treinta millónes de euros por su falta

están señalados en la resolución de la unión europea que dice que son los responsables de esta comunidad autónoma que han gestionado este asunto o sea ya están señalados

que además como hay esos responsables y esos culpables hay que pagar la multa es decir no va a ser alguien más culpable o menos porque lo digamos aquí en una proposición ya están fijados quiénes son los responsables y los culpables de esto por eso tenemos la multa porque hay culpables yo al pnv le tengo que decir dos cosas vamos a ver la situación era mala económicamente era mala sí

cuál era el motivo por el cual se planteaba aprobar

para que se crearan nuevas empresas que crearan empleo era para eso

lo cierto es que no tuvo éxito a la hora

lo cierto es que además de que nosotros ya dijimos que no lo veíamos y por eso no las apoyamos se utilizaron fraudulentamente para aplicárselas a empresas que ya existían pero que trasladaban su domicilio fiscal

que ahí es cuando empezamos a tener el lío con la rioja porque se le dan a una empresa que está en la rioja para que se pase a álava claro es que

medida fiscal ha sido como ha sido es decir incluso se aplicó fraudulentamente por lo menos en cuanto al fin y al espíritu que decía que tenía aquella medida

esta no era obligatoria esta medida

yo es que quiero recordar que en aquella época ustedes gobernaban en todos los ayuntamientos en todas las diputaciones y en el gobierno vasco con estos señores es que yo me acuerdo de la defensa que hicieron ustedes de las vacaciones fiscales en las juntas generales es que ustedes tenían un diputado foral de hacienda

en aquella época y esto no es un tema de mal uso del concierto económico esta multa por la que estamos aquí no es porque se hizo un mal uso del concierto económico

la multa es porque se han incumplido las resoluciones de la unión europea da igual que sea en tema fiscal o da igual en el tema que sea y lo que es impresentable en el partido nacionalista vasco es que sabiendo que se ha hecho mal

con prepotencia frente a la unión europea lo que no tiene ningún sentido es que hoy se siga defendiendo esa actuación

todo el mundo sabe por qué estamos aquí todo el mundo sabe que se ha intentado torear a la unión europea durante más de diez años

todo el mundo lo sabe pero hasta en la calle lo sabe todo el mundo si es que se publicaba en los periódicos

por eso estamos aquí lo que no tiene ningún sentido es que cuando llega la multa que encima tenemos que estar agradecidos porque no era la petición originaria nos la han rebajado porque si no

es que desde el lehendakari hasta cualquier cargo del partido nacionalista vasco se siga defendiendo la actuación y la culpa es de europa o porque no tiene alma o porque no se enteraban la crisis económica que había aquí que no estamos por eso no estamos porque las medidas

se incumplieron los requisitos para aplicarlas en la unión europea es más básicamente lo que se incumplió fue comunicar a la unión europea que existían

por qué no se hizo pues los responsables que gobernaban en aquellas instituciones y que estaban de acuerdo con esa eran los que lo tenían que haber hecho ni siquiera se molestaron en hacer eso y por eso la unión europea las declaró ilegales y por eso pidió que se recuperaran las ayudas

responsables políticos del partido nacionalista vasco en cada una de las instituciones han estado jugando a torear a la unión europea y con unas frases y unas actuaciones incluso en la prensa pues que no son de recibo no ya en la unión europea en ningún sitio y al final ha llegado la multa

pero una cosa es que la paguemos todos y otra que unos salgan más o menos perjudicados

no es lo mismo no es lo mismo y por eso en la enmienda transaccional que hemos firmado lo que el partido popular intenta hacer es
como siempre buscar soluciones a los problemas que han creado otros muchas gracias eskerrik asko damborenea jauna mistoa upyd

sí gracias presidenta señora gorospe tenemos que aplaudirles a ustedes encima tenemos otra vez que hacer
la rosca al partido nacionalista vasco tenemos

no van a reconocer ustedes nunca ningún error piensan ustedes que están por encima del bien y del mal que están por encima de los ciudadanos que están por encima de los intereses de los ciudadanos que están por encima de lo que dice la propia unión europea

de autocrítica no va a pedir disculpas en nombre del partido nacionalista vasco

ni una sola disculpa ni una sola autocrítica todo prepotencia y chulería que es lo que caracteriza la acción política del partido nacionalista vasco no tiene nada que decirle usted

cuando no se le ocurre otra cosa que decir que lo que tiene que hacer la unión europea es vigilar menos

pero el partido nacionalista vasco no no le va a decir nada usted el grupo parlamentario a uno de sus miembros al propio lehendakari

sin alma en lugar de reconocer lo que se ha hecho mal y decir que vamos a pagar porque es una multa que debe pagarse usted no tiene que decir nada en relación a esto

chulería pensar que están ustedes por encima del bien y del mal que son las características fundamentales

vasco quiénes han sido los responsables evidentemente en un primer momento las distintas diputaciones forales y el gobierno vasco que pusieron en marcha unas ayudas ilegales evidentemente lo he señalado ahí están los responsables principalmente el partido nacionalista vasco evidentemente

y después las distintas diputaciones forales que trataron de engañar a la unión europea que se negaron a recuperar

que pusieron trabas para recuperar las ayudas que se dijo que se habían recuperado las ayudas cuando era falso y finalmente la recuperación de las ayudas fuera de plazo y de esto es responsable el partido nacionalista vasco quién a liderado todo este despropósito pues evidentemente la prepotencia del partido nacionalista vasco dando lugar a un espectáculo absolutamente lamentable ustedes pueden reconocer el error

háganlo por una vez discúlpense ante los ciudadanos vascos que somos los que vamos a tener que pagar esta multa de treinta millónes de euros háganlo

pidan disculpas reconozcan el error ustedes son los responsables de este desbarajuste de este lío y de este espectáculo lamentable

absolutamente irresponsable y no solo eso sino que incluso años después es decir hace unos días todavía hay dirigentes del partido nacionalista vasco que vienen a decir que la unión europea tiene la culpa que no es para tanto o que lo que tiene que hacer la unión europea es vigilar menos pida disculpas

por una vez en la historia del partido nacionalista vasco pidan disculpas a los ciudadanos por lo que han hecho eskerrik asko maneiro jauna

eskerrik asko berriro legebiltzar buru andrea empezaré esta vez al revés

que se debe pagar la multa tiene usted la enmienda a mano

uste dut berdina izango duzula zuk el parlamento vasco insta al gobierno vasco y a las diputaciones forales a pagar la multa impuesta esto es una enmienda que firma el partido nacionalista vasco por lo tanto no es verdad señor maneiro que no instamos a pagar la multa

nada le recordaré que la primera vez

aparece en la normativa vasca en diciembre del noventa y cuatro en álava siendo diputado foral de hacienda presupuestos y finanzas el socialista roberto san ildefonso le vuelvo a recordar una de las razones por las que estábamos en euskadi en una situación especialmente difícil y complicada una de las tres razones la mejor política industrial es la que no se hace que lo decía

por cierto el objetivo prioritario de aquellas medidas era la creación de empleo y resultados empezando en un veinticinco por ciento y un cincuenta por ciento de desempleo juvenil a lo largo del tiempo se llegó a unos porcentajes de paro

prácticamente como en torno al seis siete por ciento hablaba usted del mal uso del concierto económico

unir con lo que ha dicho el señor damborenea el trato diferenciado con que la comisión europea trata a los diferentes estados o en nuestro caso por no ser estado y teniendo un sistema tributario propio el trato diferenciado que al débil da eso es hacer un mal uso de las capacidades

que el crédito fiscal del cuarenta y cinco por ciento la norma

que se aplicaba con carácter selectivo para la región de marsella por la situación complicada que tenían originada en torno al puerto de marsella y allí no se consideró ilegal ni que fuera

un incentivo que fuera en contra del mercado común del mercado único la misma medida en el estado francés con carácter selectivo y aquí

no se ha considerado que es una ayuda de estado y aquí sí se adoptaron esas medidas porque el gobierno vasco en colaboración con las diputaciones forales

las propuestas de holanda e irlanda hasta entonces nunca jamás medidas fiscales habían sido consideradas ayudas de estado solo

se decidió adoptar este tipo de incentivos fiscales el mal uso del concierto económico se deriva y habrá que

al estado español que histórica y sistemáticamente a venido negándose

interno a los tratados de la unión esto es a que la legislación comunitaria de mayor rango contemple la existencia del concierto económico o dicho de otra forma

de los sistemas tributarios forales distintos por tanto al estatal o de régimen común horregatik euzko alderdi jeltzaletik

han estado gobernando tres de las cuatro legislaturas en la diputación foral de álava la multa no es por los incentivos sino por los problemas en la gestión de la recuperación díganos usted a partir del dos mil siete y ustedes cuando han estado gobernando qué es lo que han recuperado

su turno de réplica lo único que nos ha revelado que ha añadido nuevo

nos llevaron al error porque ellos ya habían tenido antes una política fiscal y

se copió mal o nos dieron los papeles equivocados ellos y entonces no supimos acertar con la normativa que teníamos que elaborar yo ya me imaginaba que en el turno de réplica algo de esto iba a hacer en fin no tenía tanta esperanza de que usted hiciera

pensaba más bien que iba a persistir en el error y además teniendo en cuenta como ha sido todo este proceso teniendo en cuenta los actos de desafío de chulería con los que el partido nacionalista vasco se ha manejado con la unión europea y con los tribunales pues claro en estos momentos pedir disculpas es algo muy complicado a esa idea dogmática y de superioridad que a veces exhiben en la política pues si además le han metido estos otros componentes ahora rectificar resulta muy duro

una oportunidad de hacerlo y también ha perdido una oportunidad

ustedes fueron los responsables para hacer estas políticas fiscales los responsables para gestionarlas muy mal y

es en el tiempo y en el procedimiento llevarlo por ahí a algún órgano a algún sitio para ver qué es lo que se puede hacer usted a veces tirando de hemeroteca se puede responder políticamente a los problemas y repartiendo responsabilidades así de forma genérica usted se puede esconder un poquito más o se puede envolver

si eso lo va a hacer hágalo por lo menos documentándose a mí me parece bastante grave pensar que colaborar en gobiernos con ustedes o ustedes con nosotros o en acuerdos nosotros con ustedes o ustedes con nosotros esto signifique aceptar

porque para eso somos partidos diferentes y por lo tanto primero la responsabilidad

y no el hecho de gobernar o el de haber formado parte de los acuerdos nos lleva a compartir errores porque cuando esto sucedió ya se dijo

yo le recuerdo que este era un debate cuando las vacaciones fiscales se ponen en marcha había una cosa que se llamaba acuerdo institucional

en el marco de ese acuerdo institucional se hizo una propuesta por parte de las instituciones y

contemplaba además políticas fiscales y estos se llevaron a las juntas generales

a mi compañero roberto entonces diputado de hacienda en un gobierno de coalición con ustedes le voy a decir se llevó ese acuerdo a las juntas generales de álava lo que se planteó en esas juntas generales se dice

se debe a que nosotros en primer lugar vemos que este es un enfrentamiento abierto con la comunidad económica europea que por lo tanto este enfrentamiento se va a saldar negativamente para los intereses de la comunidad autónoma y también

no encontramos una suficiente justificación social que permita entender que lo que los empresarios dejan de pagar sirve para la promoción del empleo

y para salir de la crisis económica nosotros creemos que para la credibilidad de la comunidad autónoma para

de las instituciones forales y también del concierto económico no es el mejor camino el enfrentarnos con la comunidad económica europea

que terminen resolviendo que efectivamente estamos en una situación que no es permitida que no es tolerada

con el conjunto de los territorios que componen la comunidad económica europea y que por consiguiente tendrá que ser reorientada en su momento a su estado inicial esto se dijo el cinco de julio de mil novecientos noventa y tres la diferencia de entonces a ahora

por lo tanto era bastante más joven pero ya tenía sentido común y algo ya se les planteó votamos en contra de aquellas vacaciones fiscales que efectivamente fueron apoyadas por el partido popular y que salieron adelante después de que unidad alavesa

ellos primero dijeron que iban a votar en contra y finalmente no se atrevieron a ir hasta las últimas consecuencias esto es lo que ocurrió

esto ocurrió en gipuzkoa y ustedes solitos con la ayuda de algunos otros sacaron adelante las vacaciones fiscales no el acuerdo institucional

que lo demás sí tuvo el apoyo en esto no ustedes solos y después

por lo tanto yo no les quiero quitar la paternidad la responsabilidad y el éxito tan evidente de este sonoro fracaso de treinta millónes de euros más todos los gastos multimillónarios de bufetes de amigos suyos

señorías el grupo socialista planteó esta iniciativa con relación al desarrollo de políticas de apoyo y fomento del turismo en euskadi en septiembre del pasado año a la vista de la evolución negativa que presentaban los datos estadísticos interanuales sobre la entrada de viajeros y pernoctaciones en plena temporada de verano en euskadi unos datos que contrastaban con la evolución turística en el resto de españa en cuanto a la llegada de viajeros internacionales estamos convencidos que en la legislatura anterior con el gobierno de patxi lópez

y a pesar de la crisis económica fue lo que permitió que los datos sobre el turismo en euskadi fuesen positivos

otro elemento que sin duda ayudó a estos resultados es que no se dudaba entonces en recurrir a todos los instrumentos que resultarán eficaces para aprovechar sinergias y así por eso se cooperaba con tour españa el organismo nacional del turismo

y que tenía y tiene como misión constituir la vanguardia de la estrategia turística del estado coordinando y liderando a los actores públicos y privados del sector

hoteleros restauradores y en definitiva con todos los agentes activos del sector turístico en esta legislatura el grupo socialista ha realizado múltiples iniciativas sobre el asunto del turismo vasco

y las respuestas que recibimos entonces y que hemos venido recibiendo por parte del gobierno nos preocuparon entonces y nos siguen preocupando hoy

los socialistas hemos mantenido esta iniciativa cuya pretensión es que tratemos en el día de hoy el desarrollo de las políticas de apoyo y fomento del turismo en el país vasco el turismo en euskadi supone el doce coma cuatro por ciento del producto interior bruto en lo que respecta al volumen de empresas y empleo que representa la industria turística en euskadi podemos considerar que el turismo vasco representa unas veintidós mil seiscientos empresas y cerca

en bizkaia en término de número de establecimientos y de empleo generado

seguida de gipuzkoa con el treinta y tres por ciento y álava con el catorce por ciento

son esas actividades que están directamente vinculadas a la hosteleria

estos datos y teniendo en cuenta que el departamento de desarrollo económico y competitividad presentó su plan de acción dos mil trece dos mil dieciséis a finales de octubre del pasado año

de este año dos mil catorce podemos apreciar que desde el inicio

hasta que se da cuenta en este parlamento del plan de acción del departamento de desarrollo económico y competitividad pues han pasado diez meses con sus correspondientes etapas importantes para el sector turístico y aunque en euskadi una de sus características del sector

pues pasan hasta su presentación en este parlamento y desde que inicia la nueva etapa el gobierno vasco pasan más de dieciséis meses de gobierno

es porque también se nos dijo el pasado año en junio que en materia turística el gobierno vasco iba a trabajar con estas tres herramientas como pilares básicos

y el avance en la competitividad y el desarrollo sostenible de euskadi deben ser objetivos generales

pero también de todo un gobierno pero también de todo el gobierno vasco y el plan de actuación del departamento de desarrollo económico y competitividad

en lo que a este sector se refiere dos objetivos siete ejes y veintidós acciones para avanzar en la consolidación de euskadi como destino turístico de referencia

y los socialistas participamos de esos objetivos desde el momento

el gobierno vasco socialista puso en marcha el plan de competitividad e innovación del turismo vasco en un intento de lograr la productividad

del sector mediante la competitividad y también por medio de la innovación y por todo esto expuesto anteponer ciertos pruritos identitarios y desmantelar o no aprovechar las sinergias y plataformas internacionales o nacionales consolidadas que suponen una oportunidad

y que en su momento dieron como está demostrado buenos resultados no nos parece a los socialistas la mejor fórmula para impulsar el mercado turístico

año y medio se nos ha intentado minimizar el signo negativo de unos datos

daba el eustat respecto a la entrada de viajeros y a las pernoctaciones en euskadi

por la desfavorable coyuntura económica de los mercados y por último se nos han fiado estos datos a una lectura o análisis de los mismos de una forma

porque se nos decía que los comportamientos de los turistas no se producen como un efecto inmediato de las políticas turísticas sino que son el resultado del trabajo de varios años

por el fuerte ajuste presupuestario implantado y como un año de reflexión estratégica en el que se ha actuado en los mercados de interés prioritario en la semana santa del año dos mil trece

respectivamente con relación al año anterior al año dos mil doce

fuese una pega para la competitividad turística vasca y mientras se nos decía que la situación económica del estado español se consideraba uno de los factores que seguiría influyendo negativamente en todas las comunidades autónomas en españa en españa el turismo batía récords en el año dos mil trece

entradas de turistas internacionales contraponiéndose esta situación la española a la situación que estaba viviendo el país vasco en ese mismo año dos mil trece de forma que en euskadi se contabilizaron en entradas de viajeros

que en el año dos mil doce de turistas y también supuso un descenso en pernoctaciones

viajeros menos por tanto cuando hemos preguntado al gobierno vasco

para efectuar unos análisis un diagnóstico de la situación que atraviesa y que atravesaba el turismo en euskadi para tratar de consensuar acciones y medidas a implantar y para saber qué compromisos y qué conclusiones se habían sacado de esos contactos con el sector pues se nos ha respondido con evasivas con ambigüedades

sin planteamientos sin soluciones concretas no se ha dado respuesta por tanto a nuestras inquietudes

para fomentar el turismo era el contacto las reuniones con el sector con los agentes activos del sector turístico y como corresponde competencialmente al gobierno vasco la ordenación del turismo creemos que fijar un marco que favorezca la competitividad de las empresas turísticas

entre las diversas sustituciones en el desarrollo de las competencias que le son atribuidas es una línea de trabajo buena importante a seguir y a impulsar pero

es fundamental es clave porque estamos ante un sector que nos puede colocar en una posición de ventaja en el ámbito económico y por lo tanto lo que se necesita es el compromiso de las administraciones públicas de las empresas de los trabajadores y del resto de agentes del sector para alcanzar los objetivos fijados

pero para conseguir ese compromiso de corresponsabilidad hay que trabajar con los propios agentes del sector hay que compartir diagnósticos hay que compartir estrategias hay que plantear acciones plantear medidas que les haga implicarse no solo en la acción

porque estamos continuamente hablando de la implicación público privada del sector pero nunca hacemos planteamientos y medidas que consten económicamente cuál es la implicación real financiera del sector privado hemos considerado importante en el desarrollo de políticas de apoyo y fomento del turismo en euskadi el turismo sostenible la consecución de un equilibrio apropiado entre los diferentes objetivos implicados como el bienestar del turista el bienestar económico el bienestar social de las comunidades

requiere de políticas integradas y de liderazgo para llevarlas a cabo especialmente en euskadi por eso hemos propuesto en la enmienda que

de esta cámara hemos propuesto que las conclusiones de las reuniones de la mesa del turismo vasco dos mil veinte se integren en planes anuales de gestión y que se de cuenta esta cámara tanto tras su elaboración de esos planes como

claves para saber para pulsar cómo están los contactos del gobierno con el sector

esos contactos y por último y no menos importante y por eso también está expresado en la enmienda que hoy planteamos pedimos al gobierno vasco que evalúe de manera permanente el impacto sobre el empleo del sector turístico de la aplicación del plan estratégico del turismo vasco

a la cámara fundamentalmente por una cuestión por un afán de conocer el grado de cumplimiento de las resoluciones que este parlamento adoptó y aprobó sobre medidas de crecimiento económico y lucha contra el paro en el ámbito del turismo vasco no queremos que aquellas resoluciones de aquel pleno monográfico

queden en papel mojado tenemos que saber cuáles son las medidas las acciones evaluarlas y conocer si se han cumplido objetivos y a partir de ahí volver a adoptar nuevas medidas

han transado una enmienda porque creo que a todos nos une fundamentalmente el ánimo de fomentar y apoyar el turismo vasco muchas gracias

proposamen hau solicitamos una votación por puntos de la enmienda transada por los demás grupos y voy a pasar a

nuestra posición ante esos puntos bien ahaztu zait orri bat baina berdin du cuando se habla de la participación y la señora corcuera ha hecho mención especial a la participación del sector

se ha utilizado en el tercer punto en relación al tener en consideración las conclusiones de la mesa del turismo vasco

queda como algo participativo pero también es verdad que en esta mesa de turismo están la viceconsejería de turismo la dirección de turismo la

y los consultores de dos empresas nada más aquí no hay sector en la mesa del turismo vasco

no hay sector en cuanto al tema de dar cuenta de los planes de gestión nosotros creemos y esperamos

también podamos opinar previo a ello por lo tanto no estamos

en relación a poner la prioridad en el turismo sostenible que nosotros no hemos dicho una vez más no se habla de la participación nosotros optábamos

en un plan de turismo sostenible si realmente queremos que el
sea partícipe de la estrategia turística tenemos que contar con el sector de verdad y no solo sobre el papel eskerrik asko eskerrik asko pinedo

gracias señora presidenta buenos días señorías desde el grupo popular creemos que la proposición no de ley que presenta el grupo socialista

hoy en esta cámara pero que se presentó o

hace ya algunos meses nos parece que tiene incluso más sentido hoy que en el momento que se presentó porque en aquel momento no conocíamos cual era el criterio del gobierno en cuanto al turismo no se había pronunciado no conocíamos un presupuesto y hoy conocemos el presupuesto que da idea de las intenciones que tiene el gobierno

en un plan de turismo y también nos da idea de cuales son las prioridades del gobierno por lo tanto nosotros consideramos que si en aquel momento

hoy lo es más decir que el turismo es una industria generadora de riqueza y empleo solo en el país vasco tenemos veintidós mil seiscientos empresas dedicadas a la industria turística que generan ochenta y cinco mil empleos directos e indirectos

potente y como tal debería ser tratado en igualdad de condiciones que otros sectores industriales pero

al turismo como un sector menor casi como un sector de servicios prueba de ello es el espacio y el presupuesto que la ley de presupuestos del gobierno le dedica al turismo además desde las administraciones vascas se ha dirigido excesivamente al sector turístico hecho este que no ha contribuido al imprescindible fortalecimiento del entramado

entre las empresas que se dedican al turismo con el fin de que puedan abordar objetivos estratégicos más ambiciosos que aprovechen las sinergias

señorías no solo hay que hablar del turismo que queremos también tenemos que hablar qué quieren los turistas y por qué vienen al país vasco eso es

desde el país vasco y desde las administraciones del país vasco seguiremos en el error que llevamos arrastrando durante mucho tiempo la entrada de turistas en el país vasco en el último año como ya se ha dicho ronda las dos millónes trescientos mil entradas

a dónde vienen los turistas el sesenta y dos por ciento vienen a las capitales el sesenta y dos por ciento el veintisiete por ciento viene al interior

al litoral eso nos da idea de cual es el interés de los turistas por qué vienen al país vasco el treinta y cinco por ciento de estas entradas extranjeros el cincuenta por ciento son del resto de españa principalmente catalanes y madrileños y el quince por ciento es el turismo interno cuánto gasta un turista al día en el país vasco gasta

euros persona día y en qué lo gasta lo gasta el treinta y ocho por ciento en alojamiento el veintiocho por ciento en comidas cenas y desayunos

un cincuenta y cinco por ciento de los turistas hacen compras

principalmente productos gastronómicos cuál es la principal motivación del turista que viene al país vasco la principal la primera es la gastronomía

el paisaje y la naturaleza cuál es la principal información la fuente de información para los turistas que nos visitan es

son los datos del diagnóstico que hace el gobierno para la elaboración del plan estratégico de turismo vasco dos mil veinte y qué dice el gobierno en ese plan

dónde dice el gobierno que va a poner el interés el gobierno pone su énfasis del crecimiento del turismo en el mercado extranjero dejando a un lado

mucho más próximo donde tenemos un campo amplio para crecer y además no es un cliente estacional por lo tanto ya el plan tiene un vacío importante sorprende cuando el documento del plan se refiere a las capitales vascas quiero recordar que un sesenta y dos por ciento de los que nos visitan

y qué dice el documento bilbao es un destino

ejemplo de transformación a nivel mundial san sebastián tiene fuerza como referente gastronómico pero es que es muy caro

vitoria vitoria no tiene la fuerza de las otras dos capitales esto dice el documento este es el diagnóstico o sea de vitoria se ignora que es capital green que es capital gastronómica dos mil catorce

su patrimonio histórico cultural sus parques naturales sus paisajes tan diferentes en pocos kilómetros este es el diagnóstico que hace el documento claro con este diagnóstico qué iniciativas vamos a potenciar si vienen principalmente por la gastronomía del país vasco

tanto es así que ni la página web del gobierno vasco de turismo hace mención a la capitalidad gastronómica de vitoria dos mil catorce habla de euskadi gastronómica

que la página web del gobierno vasco que además los turistas se informan

es que si no tenemos en cuenta el diagnóstico que se hace

creemos que se puede mejorar mucho en turismo mucho y principalmente lo que tenemos que vencer es la individualidad territorial que se demuestra cada día cuando se ponen en práctica o se desarrollan estos planes en este caso

nos queda muchísimo por mejorar en materia turística

con los clásicos vicios de individualismo territorial no terminamos de entender que cada territorio de esta comunidad

y que son complementarios no rivales somos complementarios y si realmente el turista viene aquí por la gastronomía y por los paisajes y la naturaleza tendremos que incentivar o poner énfasis en aquellas iniciativas

vender las tres capitales no una y las otras pues

peros negativos como decía el gobierno ha elaborado un plan de turismo decir que es un documento denso y farragoso donde cuesta ver

dentro de las más de cien iniciativas dónde o qué es lo prioritario para el sector porque entendemos que el sector tiene que ser

la administración está para apoyar para potenciar

tenemos que hacer es generar un sector fuerte con estructuras fuertes y potentes

tendremos que tener estructura que pueda recoger esos visitantes que van a venir y que además generemos iniciativas que hagan que esos visitantes

en el país vasco porque tenemos una baja pernoctación por lo tanto tenemos flaquezas importantes debilidades que debemos corregirlas

por lo tanto señorías nosotros creemos que la enmienda que hemos firmado es un principio porque puedo entender que hay muchísimo que hacer entendemos que tiene que haber unas iniciativas anuales donde se fijen las prioridades y que como cualquier plan este plan también hay que evaluarlo y que esa evaluación será lo que nos marque qué es lo que

que no es el paradigma de modificar determinados aspectos del turismo que son necesarios pero es un camino a avanzar nosotros desde luego entendemos que hace falta muchas más cosas pero esta enmienda en principio

presidente andrea sailburua legebiltzarkideok eguerdi on la verdad es que después de tantos meses tras la presentación de la propuesta original me parecía una buena idea lo que había hecho la señora corcuera y es proponernos un testo

insisto al de la propuesta original

razonable en la medida en que han pasado muchos meses y que a partir de ahí como yo creo que otros portavoces también lo han puesto de manifiesto han ocurrido algunas cosas los datos evidentemente

el plan estratégico del turismo vasco dos mil veinte lo que sí me decepciona un poco es que a pesar de haber cambiado su texto

el discurso y bueno me decepciona en la medida en que tuvimos un debate ya sobre esta misma cuestión

precisamente durante la presentación por parte de la consejera arantxa tapia del referido plan y no se si

arrastrados a reproducir de alguna manera el debate que tuvimos a principios

yo la verdad es que iba a ser muy breve pero bueno estoy obligado también a poner un poquito en valor y a poner algunas referencias de lo que es el plan estratégico porque evidentemente

adoptado y en coordinación con el sector eso es algo muy importante también con el resto de las instituciones y por tanto es un plan integral

donde se pone de manifiesto la colaboración pública pública pero también la colaboración público privada porque se hacen toda una serie de consideraciones

no las hiciera no las estuviera desarrollando y precisamente sí las está desarrollando yendo a la enmienda que

lógicamente desarrollando lo que estoy diciendo nosotros

pero insisto lo que no vemos muy coherente es que nosotros estando de acuerdo con todo lo que o con algunas cosas de las que se dicen desde esta tribuna se trate de aparentar o decir que el gobierno vasco no las sigue cuando sí

los cuatro puntos han sido de alguna manera ya explicados por algunos portavoces yo lo que sí quiero decir es que evidentemente nuestra estrategia de turismo para el desarrollo del sector turístico en euskadi pues sí que es un poco diferente en relación a

en el sentido de que los tiempos cambian sucesivamente en las políticas en general de desarrollo económico como en otras también pero bueno

y a los nuevos retos que se van presentando sí hay un aspecto si se quiere un poquito más sustancial y es que nosotros we dont need spain ahí insistía y lo ha dejado caer

texto original aunque ahora lo ha retirado pues bueno que tenemos que de alguna manera estar supeditados a la estrategia de turespaña nosotros preferimos colaborar y no estar supeditados como una estrategia que decidió el anterior gobierno con aquel lema insisto del primero need spain well we dont need spain lo cual no significa que no colaboremos

pero tenemos una estrategia propia y diferenciada y yo creo que la señora pinedo

en unos criterios que nosotros coincidimos yo muy rápidamente a la señora ocariz decirle que el gobierno vasco ha apoyado plenamente y apoya plenamente y es público y notorio incluso presupuestariamente la capitalidad gastronómica de vitoria gasteiz eso sí sí se ve pero se ve no solo digamos desde un punto de vista

presupuestario se venden las tres capitales y se vende país de una manera integrada con su diversidad y con su complementariedad y si

merma mayor en relación a los demás territorios es porque depende más del turismo estatal entonces

hay que recuperarlo algunos factores no dependen de nosotros depende mucho del poder adquisitivo y de la situación económica general que tienen en españa pero lo que sí pretendemos es incorporar álava por qué no el turismo

que se sitúa principalmente en donosti gipuzkoa y en bilbao y creemos que es una buena estrategia bueno yo decir que

como ya dijimos en la comparecencia de la consejera nos parece un plan completo nos parece un plan bien concebido bien pensado que evidentemente

los retos que tiene delante el sector turístico vasco para los próximos años nosotros evidentemente estamos de acuerdo con que todo eso está sobre el papel y todo eso bueno necesita lógicamente un acompañamiento presupuestario y lógicamente

en este caso anualmente de los diferentes parámetros que están incluidos en el plan pero evidentemente tienes que tener primero un plan porque sino tienes un plan es muy difícil aplicar

y nosotros evidentemente le animamos o casi casi diría que no hace falta animarles porque

a que desarrollen plenamente este plan en función de los objetivos generales objetivos específicos ejes y medidas concretas que se plantean es un plan que está inserto en la estrategia de competitividad país euskadi que desarrolla el gobierno vasco en su conjunto pero sí me va a permitir la señora pinedo un comentario en relación

porque es de alguna manera no sé si un eje pero es una idea que evidentemente está incluida en el plan pero yo sí le quiero aportar una acción o medida práctica insisto que está en el plan

pero sí le quiero aportar digamos que un dato y es que euskadi ya está en la organización mundial del turismo está inserto y

bueno a esa demanda que me parece no solo legítima sino que la comprendemos y no solo la comprendimos sino que nosotros también estamos absolutamente de acuerdo el gobierno está respondiendo y estamos de acuerdo porque evidentemente uno de los atractivos turísticos de euskadi es la naturaleza no tanto el sol es lo que tenemos pero sí la naturaleza entonces evidentemente si

evidentemente la tenemos que cuidar por lo tanto de ahí que nosotros compartimos plenamente

que usted expresa yo quería subrayar también la señora ocariz bueno

al sector empresarial turístico está contemplado en el plan si usted repasa cuáles son los factores de competitividad a desarrollar

de concepción e implementación de toda la estrategia pues ahí tenemos el desarrollo empresarial basado en la innovación

etcétera bueno todo está contemplado entonces insisto son ideas que nosotros compartimos

en el propio documento que no sé si conviene repetirlo pero bueno tiene

la superación de la crisis la generación de riqueza la generación

reforzar la competitividad precisamente de las empresas turísticas incidir sobre la demanda e impulsar también el modelo socio económico de euskadi

hay objetivos específicos como es avanzar en la consolidación de euskadi como destino turísticos con una serie de ejes de fortalecer la industria turística la señora ocariz se ha referido a ello optimizar el marco institucional y de gestión que usted también se ha referido y estoy completamente de acuerdo y bueno yo creo que hay colaboración interinstitucional y bueno no sé si será necesario pero igual para una

me dejo lo qué es la visión que tiene este gobierno en relación con su estrategia de turismo porque la tiene y eso es bueno es una estrategia completa

está desarrollándolo ya no solo desde que lo ha concebido sino

y nosotros desde el punto de vista del fortalecimiento del sector turístico en general y de esta estrategia la verdad es que nos tenemos que mostrar como optimistas

presidenta se nos decía que había habido alguna sorpresa por parte de la propuesta que se plantea o no sé la propuesta de la enmienda el caso es que

en septiembre del año dos mil trece que por los avatares de cómo se articulan las iniciativas para tratar en este pleno pues ha tocado hoy en el día de hoy y

no había ni plan de acción del departamento de desarrollo económico y competitividad no había ningún plan de marketing no había ningún plan estratégico en ciernes así que

en esta cámara y por eso presentamos la iniciativa y lo ha dicho anteriormente hemos seguido presentado iniciativas respecto al tema

han sido ambiguas poco concretas no se nos han especificado ni cuántos contactos ni con quién se ha mantenido contactos en el ámbito del sector turístico y por lo tanto

quedan muchas muchas cosas por conocer por saber por plantear por decidir y en eso si esta iniciativa

a plantear acciones y medidas que puedan resolver los problemas que coyunturalmente se van planteando por parte del sector turístico pues bienvenida sea esta humilde iniciativa y esta

que se ha ensalzado la gestión turística del gobierno vasco socialista el gobierno de patxi lópez faltaría más que no lo hiciera yo cuando a veces no lo hago me lo dicen pues bueno

que lo han venido reflejando el turismo en los años de gestión del grupo socialista del partido socialista

históricos de crecimiento en positivo magníficos pero no es achacable exclusivamente al gobierno sino la estrategia que se planteaba que era de contacto permanente con el sector turístico

para plantear esa estrategia en común para tirar del carro del turismo vasco

para que esos datos fuesen absolutamente positivos e importantes y tirasen del crecimiento

de euskadi fue que se aprovecharon las sinergias de las plataformas nacionales e internacionales que se tenían a disposición en el ámbito turístico y a los socialistas nunca nos ha dolido en prendas hablar de españa igual a algunos les irrita la piel pero es que a los socialistas

de marketing del turismo tiraba y acarreaba de este sector

pero por qué nos vamos a poner una venda en los ojos y no seguir colaborando participando de estas estrategias y como digo sean nacionales o sean internacionales para los socialistas a veces priorizar los temas identitarios suponen un problema

es el caso y el tema del turismo no está para que se le planteen problemas los turistas cuando llegan no quieren problemas quieren tener un territorio en este caso euskadi con unas capitales o unas localidades que les favorezcan su estancia en las mismas y para eso hay que ser atractivos y no plantear ni dudas ni incertidumbres

y a mí hay algo que sí me gustaría destacar y es que estamos ante una coyuntura muy importante para el tema

y hemos dicho que el turismo se ha consolidado aquí en el país vasco como uno de los sectores económicos más dinámicos y que está aumentando su peso especifico en el producto interior bruto

ese tirón que puede tener el turismo para la cuestión del empleo en el país vasco

trabajadores y trabajadoras en el sector por lo tanto aprovechemos y si hicimos nos pasamos aquí un día en esta cámara en este pleno monográfico con un tema monográfico el crecimiento económico y el empleo en euskadi

aglutinar resoluciones entorno a los más variados ámbitos incluido también el sector turístico creo que es nuestra obligación como responsables políticos el instar a esta cámara

esas resoluciones me parece que era importante que se había quedado en el tintero de la anterior iniciativa original que los socialistas habíamos presentado y creo que es un buen factor el haberlo incluido

para dar tiempo a que vayan llegando los compañeros para votar

me sulfura ni nada por el estilo sí señora corcuera digo

simplemente yo pido respeto la respeto pero pido el mismo respeto

y lo que sí quiero insistir es que nosotros tenemos por nuestras propias características unas condiciones para poder ofertar un turismo propio y diferenciado y puestos bueno pues a señalar algún tipo de ejemplo le insistía en el que nosotros we dont need spain es porque

bastante más sinergias en muchos sectores y como producto turístico por ejemplo estoy hablando por ejemplo del surf no solo ya del clima gastronomía que por ejemplo lo que podemos tener con torremolinos o con fuengirola

y bien pero bueno estamos hablando del sector turístico vasco